javier ruiz de arbulo cerio jon azkue manterola eva juez garmendia patxi elola azpeitia eta aitor mikel urrutia

nos sorprendió una nueva operación de la guardia civil en cataluña no sé si nos sorprendió realmente o también nos la esperábamos

quien vaya a defender ni la práctica política

de convergencia democrática de cataluña no vamos a ser desde esta bancada quienes vamos a abandonar una postura de absoluto rigor e inflexibilidad contra la corrupción porque más allá

el sistema político actual pensamos que sobre todo incide en un sistema de castas en un sistema de privilegios para algunas élites en detrimento de los derechos de las clases populares y en ese caso también pedimos todo el peso de la ley contra los corruptos pero no solo contra los corruptos de convergencia también contra los corruptos del partido popular que están a día de hoy en la calle

de tal calibre pero si cabe alguna duda porque de por medio esta el poder judicial cuando entra en una operación de este tipo cuando entra la guardia civil

una motivación política detrás de esa operación y es una motivación política contra el proceso independentista puesto en marcha en cataluña no nos queda ninguna duda

degenerazio demokratiko hori ante la degeneración

del estado español solo cabe procesos independentistas proceso independentista en cataluña y proceso independentista en euskal herria

una transformación democrática real una democratización de nuestra sociedad con su pleno sentido eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna

y notorio que los socialistas nos oponemos a la reforma que el partido popular ha introducido en la ley del tribunal constitucional para dotarlo de capacidad

y nos oponemos frontalmente y no lo hacemos porque no queramos que las sentencias del constitucional sean atendidas lealmente por las instituciones afectadas

un horror un error por el propio enfoque de la reforma y un horror por el momento y por el procedimiento elegido

se ha hecho a uña de caballo en el último minuto de la legislatura y a través de una proposición de ley del grupo popular ni siquiera la ha impulsado el gobierno

que es lo que demandaría cualquier cambio en una institución de la importancia del tribunal constitucional no pero no se ha hecho así

para tramitarlo a la carrera invocando urgencias que se anticipaban a decisiones que pudieran adoptarse por parte de las instituciones embarcadas en cataluña en la aventura de la secesión y aquí viene el error fundamental de la reforma aprobada porque la consecuencia de esta reforma es desnaturalizar

que es o debe ser el supremo interprete de la constitución no su garante último como se pretende con el cambio exprés de su ley orgánica realizada la semana pasada y la distinción fundamental aunque no extraña que al partido popular se le escape es importante

a su favor todo asunto político que no fuera de su gusto ahí tenemos sus recursos contra la modificación del código civil que sancionó la igualdad de derechos entre personas

contra el establecimiento de una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo o contra el estatuto de autonomía de cataluña aprobado en el dos mil seis actuación de la cual se han derivado tantas y tantas consecuencias no precisamente positivas

que el propio tribunal constitucional ha tenido que precisar en alguna sentencia que no es su cometido solventar asuntos políticos

dentro de los principios de la constitución pues bien el partido popular no se conforma con eso sino que ahora ha querido dotar al tribunal de unas potestades ejecutivas

y además no oculta ni mucho menos su intencionalidad política con esta reforma no se trata de corregir una situación de hecho porque no puede decirse que las sentencias del constitucional se vengan incumpliendo sistemáticamente no es cierto ni que el propio tribunal

lo que se pretende es anticiparse a las nuevas situaciones como se dice en la propia proposición de ley del pp lo que nos lleva a una reforma preventiva y dirigida

de instrumentos para responder a eventuales actuaciones de las instituciones de cataluña que pretendan actuar fuera de la legalidad para aclarar posturas los socialistas no estamos en contra de que se mejoren los instrumentos que ya tiene en su ley el tribunal constitucional para hacer efectivas las sentencias nuestra objeción se centra en el modo en el que se aborda esta modificación legal y en el contenido de alguna de esas supuestas mejoras

y eso es lo que ocurre cuando en el nuevo artículo noventa y dos de su ley orgánica

sustitutoria de sus resoluciones suspendiendo sin proceso previo

o dictando las medidas necesarias para asegurar que se cumplan lo que se hace es alterar la naturaleza del tribunal constitucional haciendo que pase de árbitro e intérprete a policía de la constitución y eso no lo décimos solo los socialistas lo están diciendo muchos

expertos juristas como muestra voy a leerles la conclusión de un insigne jurista ex director del instituto de estudios constitucionales ex vicepresidente del tribunal constitucional

supongo que les suena dice el señor llorente

es cuestionable y además dudosa su eficacia para frenar el independentismo catalán pero lo que es segura es su capacidad para echar sobre el tribunal constitucional una carga política que terminará por aplastarlo esto es lo que ha dicho junto a otros rubio llorente creo que no haría falta decir nada más bueno tendría que felicitarme

se preocupe hoy tanto por el adecuado funcionamiento de uno de los órganos fundamentales del estado como es el tribunal constitucional es una buena noticia

no son de defensa del tribunal constitucional precisamente son puramente instrumentales lo que le mueve a bildu

no es defender el papel que le corresponde al tribunal constitucional y el correcto funcionamiento del sistema democrático

para su proyecto político lo que le preocupa es que esa desnaturalización de las funciones del tribunal llegue a utilizarse para frenar los pasos unilaterales hacia la secesión

de democrático tiene bien poco porque no puede ser democrático lo que se hace fuera de la ley y despreciando los procedimientos establecidos aunque se cuente con una mayoría de parlamentarios los socialistas sin embargo sí queremos que funcionen adecuadamente los órganos del estado sí queremos un tribunal

y lo que no cabe en la carta magna y de arbitrar los conflictos entre los poderes del estado porque entendemos que eso mejora y fortalece el estado democrático que tenemos

que debieran estar ustedes los primeros muy interesados en ello porque entre otras cosas si se pudieron presentar a las elecciones que les trajeron a esta cámara fue gracias al tribunal constitucional

anulando un auto del tribunal supremo en sentido contrario en consecuencia mi grupo va a mantener la enmienda de totalidad que hemos presentado

hace de un órgano esencial de la arquitectura constitucional de forma apresurada y para un fin muy concreto y específico y que estamos totalmente en contra de darle al tribunal constitucional

buenos días una vez más este parlamento señorías

y también está el parlamento vasco para debatir sobre aspectos como los de hoy se somete a consideración de esta cámara de control al gobierno sino que hoy venimos a hablar de otras cosas sorprende s verdad como decía el señor pastor

que quienes no solo no creen en el tribunal constitucional y quienes no solo no creen

el estado social y de derecho en el que se articula españa muestren no preocupación por las formas en las que el tribunal funciona o los poderes del estado funcionen en relación al tribunal constitucional no solo preocupación sino lo que quieren ustedes es cargárselo y entiendo que

cualquier oportunidad es buena pero nos vemos una vez más en la obligación en esta cámara de insistir sobre lo obvio de reivindicar lo obvio de proteger lo obvio en definitiva de intentar hacer efectivo lo obvio y con su permiso señor arraiz voy a derivar el debate otra vez en el objeto

que no es debatir sobre la independencia de euskal herria ni de cataluña que no es debatir

debatamos sobre separación de poderes y debatamos sobre la buena salud

pero de lo que estamos hablando aquí es de una reforma de una ley orgánica para que un tribunal pueda hacer efectivas sus resoluciones no estamos hablando de otra cosa no se está hablando

para que las resoluciones para que las sentencias del tribunal constitucional sean efectivas

que por cierto hacen otros estados también sobre los que nadie or lo menos en esta cámara yo no he oído

que tiene herramientas jurídicas también para hacer efectivas las resoluciones de su tribunal constitucional

es decir lo hacen países de nuestro entorno que probablemente para eh bildu no sean democráticos tampoco pero lo hacen países de nuestro entorno de occidente

también las de los máximos órganos de interpretación constitucional puedan hacer efectivas sus resoluciones pero al final la madre del cordero i me permiten la expresión o el origen de toda esta historia es efectivamente

hay un cuestionamiento del estado democrático de derecho que significa españa que ustedes lo cuestionan cuestionan tanto

que estamos peor que hace cuarenta años parece cierta nostalgia señor arraiz sus manifestaciones porque

peor que hace cuarenta años quizás ustedes estén peor que hace cuarenta años eso es cierto

es un estado democrático y de derecho que con la constitución española

articula la convivencia de los vascos que ustedes rechazaron desde el principio

y que otros intentaron derribar a base de violencia y afortunadamente ha vencido el estado democrático de derecho

cargárselo y por lo tanto entiendo que si algún sentido tiene esa manifestación de que estamos peor que hace cuarenta años

o es meramente una descripción de cuál es su situación y como cuestión previa también orque creo que hace falta decir la legalización de sortu dicho de una manera poco técnica a través

yo no creo que estuvo sustentada en intereses políticos ue los había en torno a esa resolución judicial sin duda

se produce en los términos que se produce porque ustedes hicieron lo que tenían que hacer y si hubieran tenido que

aceptaron el ordenamiento jurídico aceptaron lo que

de la épica revolucionaria a la aceptación de las normas

ustedes en cualquier caso para centrar

lo que esta reforma pretende conseguir es que el tribunal constitucional

de la constitución española para hacer ejecutar lo juzgado que la ley orgánica antes de la reforma no lo contemplaba

garantice algo tan importante tan importante en un estado democrático de derecho como que la tutela judicial efectiva

sea una realidad también para las resoluciones del tribunal constitucional se trata con esta reforma de que el tribunal constitucional

para que las resoluciones tengan efecto se trata de reforzar y hacer efectivo

lo que ya contemplaba la ley orgánica del tribunal constitucional antes de la reforma en su artículo noventa y dos

de sentencias que lo hacía de una manera indiciaria que era una

de principios por lo tanto por lo tanto

este es el origen de la discrepancia se trata de que el estado de derecho dote de herramientas al máximo órgano al tribunal constitucional para

judicial efectiva de los ciudadanos y de los poderes públicos de los ciudadanos y de los poderes públicos insisto herramientas que ya de las que están dotados también estados poco sospechosos supongo a ustedes supongo que no porque son también sospechosos como alemania austria italia etcétera etcétera

de cuál es el objeto de la tremenda reforma qué es lo que dice esta reforma que se quiere cargar la división de poderes que pretende poner patas arriba el estado de derecho qué es lo que dice la reforma

qué es lo que dice la norma escrita y qué es no solo las interpretaciones que ya muchas veces nos interpretan

y fíjense dice que para lo no previsto expresamente

será aplicable supletoriamente la ley de jurisdicción contencioso administrativo que levante la mano el primero que vea dónde se carga alguien la separación de poderes por favor en particular el tribunal constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad

y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo presten con carácter preferente y urgente como hace cualquier otro tribunal en caso de advertirse

que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida se dota al tribunal constitucional de herramientas para solucionar esta anomalía cuáles son esas herramientas imponer una multa coercitiva

que incumplieren las resoluciones del tribunal esto le tiene que preocupar al que quiera incumplir las resoluciones del tribunal constitucional

en sus funciones el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal como por cierto hacen otros muchos tribunales ordinarios

es decir que también el tribunal pueda requerir la colaboración del gobierno de la nación a fin de que en los términos fijados por el tribunal

el cumplimiento de las resoluciones no sé no parece

la separación de poderes ni el estado de derecho y para terminar señora presidenta el señor pastor hacía algunas referencias a otros bueno a gente que se ha pronunciado en contra de esta reforma

la libertad y el estado de derecho que hay algunos que sí les parece bien otros les parece mal y se pronuncian pero es que

a favor de esta reforma no solo el foro judicial independiente se ha manifestado sino que también importantes catedráticos de derecho constitucional

que nadie proyectará una sombra de sospecha al menos sobre alguno de ellos sobre vinculaciones políticas no precisamente con el partido popular

de carreras o jorge de esteban se han pronunciado también a favor quiero decir

menos bien regular o mal pero lo que es una realidad y lo que parece sorprendente es que el tribunal constitucional

herramientas no se hubiera dotado de herramientas para hacer efectivas sus resoluciones parece sorprendente pero eso sucedía

y a quienes más les preocupa que esto sucediera o deje de suceder mejor dicho

a no cumplir con las sentencias judiciales y no estamos hablando de ciudadanos particulares que también estamos hablando de poderes públicos que son además representantes del estado

también de las prescripciones constitucionales los que se oponen de una manera más furibunda a esta reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional y eso debería
de hacernos reflexionar muchas gracias eskerrik asko sémper jauna mistoa

sí muchas gracias presidenta buenos días buenos días a todas y a todos señor lehendakari

del tribunal constitucional impulsada y aprobada por el partido popular entendemos que la reforma planteada por el partido popular es además de innecesaria

inconstitucional innecesaria porque ya hay ya había instrumentos legales para hacer cumplir las sentencias del tribunal constitucional objetivo enarbolado por el partido popular para justificar la reforma llevada a cabo y ya había instrumentos legales de sobra porque contamos con el auxilio de todos los jueves y tribunales de españa y porque además en el código penal

y es posiblemente inconstitucional dado que tal como se recoge en el artículo ciento diecisiete punto tres de la propia constitución la potestad jurisdiccional

por las leyes por tanto la reforma es innecesaria y como digo seguramente inconstitucional y está basada en motivos políticos y electorales el pp lo que pretendía el señor sémper

hoy aquí era intentar engañar a la sociedad española haciéndole creer que no existían instrumentos para actuar

la generalitat de cataluña pretendía quiso y quiere hacer creer que se era contundente cuando realmente lo que se ha impulsado y aprobado es una chapuza y un disparate jurídico analicemos las formas y el fondo

la reforma del partido popular se lleva a cabo no a través de un proyecto elaborado por el gobierno de españa sino mediante una proposición de ley suscrita únicamente por el partido que lo sostiene

la reforma del partido popular se tramita por el procedimiento de urgencia con tramitación directa en lectura única minusvalorando de ese modo no solo el trabajo de nuestros representantes sino incluso depreciando el propio congreso de los diputados

cualquier reforma que afecte a una institución como el tribunal constitucional debería llevarse a cabo mediante un amplio acuerdo político y después de un riguroso debate técnico pero

ha antepuesto sus propios intereses de partido en cuanto al fondo la reforma del partido popular es una amenaza para el propio tribunal

de una carga política que le perjudica notablemente la reforma tergiversa y trastoca el sistema constitucional entero la reforma es además ineficaz es verdad que hay sentencias del tribunal constitucional que no se han cumplido pero

es el ejecutivo y no se puede pretender que lo hagan los magistrados del tribunal constitucional se nos dice que el fin es encomiable garantizar el cumplimiento

para alcanzar ese objetivo el tribunal constitucional tiene ya la potestad de imponer multas coercitivas a quienes desobedezcan sus resoluciones ya las tenía

la cuantía de las multas establece la posibilidad de que

esto es importante el tribunal constitucional suspenda de sus funciones

rebelde a un cargo público algunos conceptos que deberían estar claros el tribunal constitucional tiene la función de defender jurídicamente la constitución mientras que al jefe del estado o al gobierno

o existencial de la misma el artículo noventa y siete de la constitución atribuye al gobierno la defensa del estado como escribió recientemente el señor javier tajadura el gobierno alega que con su propuesta de dotar al tribunal constitucional de la facultad de suspender en sus funciones a una autoridad rebelde se cubre una laguna jurídica

tajadura el código penal ya recoge los delitos de prevaricación y desobediencia y otros más graves como la sedición los jueces del orden penal podrían por tanto

y por otro lado el gobierno ya tiene la competencia para actuar directamente

la propuesta es un brindis al sol y una medida absolutamente ineficaz y una chapuza el gobierno de españa ha pretendido dar una imagen de contundencia pero realmente lo que ha llevado a cabo es una dejación de funciones vergonzosa y cobarde el gobierno de españa pretende trasladar al tribunal constitucional

así se convierte al tribunal en un actor político y además en un actor político ineficaz no solo no resuelve el problema por lo tanto sino que lo empeora lo que quiere hacer el pp

convertir al tribunal constitucional en un órgano seudopenal y esto es efectivamente hacer las cosas rematadamente mal cuál es la alternativa

que nosotros hemos venido defendiendo estas últimas semanas y también en el propio congreso de los diputados en primer lugar evidentemente profesionalizar y despolitizar la justicia en españa

consejo general del poder judicial están a día de hoy colonizados por los partidos políticos por el partido popular por el partido socialista por el partido nacionalista vasco

es mantener la reforma del tribunal constitucional del pp en la parte relativa a la clarificación de las funciones del tribunal para hacer cumplir sus resoluciones pero a continuación extraer todas las disposiciones sancionadoras del texto y crear una referencia a un nuevo delito y un procedimiento especial en la jurisdicción penal conservando todas las características del procedimiento penal incluidas las garantías para el procesado

y permitiendo apartar a los cargos públicos de forma temporal pero con las debidas garantías garantías es técnicamente mucho más adecuada porque se crea un delito especial de incumplimiento de resoluciones del tribunal constitucional con lo cual es la jurisdicción penal

da la competencia a la sala segunda del tribunal supremo que no se caracteriza por tener carga de trabajo en cuanto a la instrucción de procedimientos esto es lo que se podría haber hecho y se podría haber planteado también la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para crear una nueva medida

que no es ninguna de las tres existentes citación detención y provisión provisional para que el juez penal del tribunal supremo sobre el que recaiga el procedimiento

mientras instruye el procedimiento por el delito de incumplimiento de resoluciones del tribunal constitucional esta nueva figura por cierto

en pintura en nuestro ordenamiento pues al crearse en la ley de enjuiciamiento criminal de forma general

para cualquier procedimiento penal así que podría aplicárseles a sus imputados es la única forma técnicamente correcta de suspender a un cargo público lo demás son chapuzas jurídicas que no interesan a nadie en todo caso además y en este caso esa decisión la valoraría en cada situación

del tribunal supremo no sería de aplicación automática en todo caso en nuestra enmienda hemos pretendido ir al fondo de la cuestión

un problema que existe en españa como es el incumplimiento de la legalidad vigente y la pretensión de determinados dirigentes de caminar

por encima de las leyes obviando que la ley debe ser igual para todos y que sin ley

de ahí la enmienda de totalidad que nosotros hemos presentado y que dice lo siguiente el parlamento vasco declara que sin ley no hay democracia que la ley debe ser igual para todos y que todos debemos respetarla y cumplirla incluidos los representantes del estado las instituciones democráticas y los representantes de los ciudadanos

demasiados no entienden que sin ley no hay democracia y que la ley siempre debe cumplirse esto ya digo que demasiados no lo entienden

eh bildu así lo ha demostrado el señor arraiz en su intervención y así lo demuestra su trayectoria política así lo ha demostrado al citar

lo demuestra él y sus compañeros de viaje todos los días del año que efectivamente no entienden que sin ley no hay democracia y que la ley

por otro lado ciertamente llama la atención que quien no ha respetado los más básicos principios democráticos

lecciones de democracia el señor arraiz hablaba de degeneración democrática y no hay mayor degeneración democrática que apoyar o justificar los asesinatos de conciudadanos esa es la mayor degeneración democrática que se ha producido en españa en las últimas décadas por lo tanto

de los representantes de eh bildu y es lamentable y penoso

es responsable de la mayor de las corrupciones es decir la persecución de los que piensan distinto

un discurso contra la corrupción en fin ya digo

es una chapuza jurídica y además una chapuza jurídica ineficaz las cosas hay que hacerlas bien y evidentemente en españa hay un problema de que la ley en demasiadas ocasiones se pueden cambiar las leyes pero hay que hacerlas bien y no de la forma en que lo ha hecho el partido popular por todo ello mantenemos nuestra enmienda y tengo que decir también que estamos básicamente de acuerdo con la enmienda planteada

bertan en el preámbulo en la motivación de esta ley orgánica de reforma a su vez de la ley orgánica del tribunal constitucional es que el pp no se oculta va de cara pero es que lo dicen expresamente dicen

contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad obliga

para que la garantía de efectividad sea real o sea una ley para un caso concreto además se sitúan

en el espacio y también en el tiempo porque dentro de las modificaciones y digo tiempo

de una cita electoral un gobierno que quedará en funciones hasta que se constituya el siguiente gobierno tras la constitución del congreso etcétera etcétera o sea en ese interregno de vacío

también contemplan esa situación y dicen

de las autoridades o empleados públicos o encomendar al gobierno de la nación aún en funciones que puede suceder entre el veinte de diciembre

no sea que el parlamento catalán haga algo que no debe aún en funciones se le encomienda al gobierno esa

espacio político no quieren abordar la cuestión de fondo que es conflicto político tampoco se atreven a llevar la cuestión

evitan el debate y por la puerta de atrás lo que hacen es adecuar

y están haciendo una cosa peor están atribuyéndole

conflictos políticos porque el partido popular el partido socialista obrero español

que tienen relación con el denominado tema catalán todos osotros también aunque sea a distancia tenemos

un conflicto político que resolver y ustedes evitan ir al senado evidentemente y utilizan el atajo del tribunal constitucional beno eskubideak zaintzea omen da

benetan gure arazo politikoak horren arabera ebatzi ahal izateko queremos reglas de juego democráticas iguales para todos para estar en igualdad de condiciones

y por eso nos preocupa sobremanera lo que hace el estado español con sus instrumentos entre ellos el tribunal constitucional para emplearlo en contra de la propia democracia en contra

espainiar estatuaren egoera hori da espainiar estatuaren izaera gaur gaurkoz y no creo que tenga nada que ver con cómo podemos estar nosotros como partido político me puedo esperar esa afirmación esa interpelación de cualquiera menos de un representante del partido popular del país vasco me va a permitir

herritarrek erabakitzea eta herritarrek erabakiko dutena errespetatzea hori da eskatzen duguna fue el pp el partido popular el que dijo que

tanques a cataluña va a mandar jueces esa es la decisión política que ustedes han tomado utilizar la judicatura utilizar el poder judicial para tratar de no solucionar un problema político para tratar de aplastar un problema político

de hacer esa es la forma de entender la política por parte del partido popular y por parte del estado español hortik ere

ez dago margenik ez dago ibilbiderik no hay margen democrático para hacer el debate

en el estado español no hay recorrido democrático no hay recorrido democrático hay amenazas y agresiones pero no hay recorrido democrático para ese debate

nos lleva a tener que tomar nuestras propias decisiones y en este contexto histórico en el que vivimos no pueden ser otras que proceso independentista proceso independentista en cataluña

sí gracias presidenta brevemente bien aprovecho este tiempo de réplica para reafirmar el anuncio que hizo el partido socialista

de forma que sea el propio tribunal constitucional quien determine si esa reforma exprés y las nuevas potestades que les da el pp en el artículo noventa y dos son compatibles con la función interpretativa y arbitral

no valen analogías con los tribunales ordinarios el tribunal constitucional no es un tribunal ordinario es más ni siquiera es un tribunal al uso eso se diseñó

con una función de intérprete y árbitro de la constitución no con la de un tribunal común por lo tanto no se le pueden aplicar las mismas reglas y además para aplicar

y está el propio ejecutivo por lo tanto aquí se busca una justificación extraña a las funciones del tribunal

miembros del propio tribunal constitucional eso es pervertir el propio tribunal y además es echarle encima una responsabilidad política que no les corresponde

porque nos guste o no el problema de la secesión de cataluña se aborda así desde la aplicación de la ley y desde la política desde la política con mayúsculas desde la política inteligente desde la política que soluciona problemas y no crea otros nuevos y mucho de eso es uno de los problemas en los que ustedes están cayendo

dentro del programa electoral con el que los socialistas concurriremos a estas elecciones generales llevamos un compromiso

de reforma de todos los órganos colegiados para eso que se llama la descolonización política de las instituciones del estado una propuesta que lleva

importante de autocrítica que nos hacemos también nosotros pero es evidente que no se ha dado por parte de las instituciones del estado una imagen muy edificante en muchas ocasiones y por eso planteamos que las instituciones del estado las que se encargan del control político sean lo más neutras posibles neutras absolutamente es imposible es decir

por ley con la colonización política del tribunal constitucional del consejo general del poder judicial

del banco de españa del tribunal de cuentas y de otros tantos y tantos organismos reguladores eligiendo sus miembros al margen de la actual presentación de candidatos que ahora mismo establecen los diferentes partidos políticos esta es la reforma que necesita de verdad el tribunal constitucional la que le refuerce y la que le devuelva el prestigio y la presunción de neutralidad

no la aprobada por el pp porque es verdad lo que le recordaba yo y lo que le recordaba el señor maneiro es que se han saltado ustedes todos los procedimientos no estamos hablando

no hay un informe jurídico que lo avale no ha pasado por el consejo de estado ni siquiera es una propuesta del gobierno es una propuesta hecha de prisa y corriendo con carácter preventivo para intentar aparentar que se frena un problema político muy serio que existe en cataluña

de esta manera créame señor sémper eskerrik asko pastor jauna

en otros debates que no son el objeto de la proposición no de ley empezando por el señor maneiro y

en relación con el señor pastor cuando hablan del procedimiento etcétera etcétera la aprobación a través de lectura única

no es la primera vez se ha modificado la ley orgánica del régimen electoral general se han modificado la propia constitución a través de lectura única

y cuando lo hace otro está muy mal verdad señor pastor en cualquier caso yo también interpreto que la intervención del señor maneiro responde a cierto complejo ante los nacionalistas

me ha llamado poderosamente la atención también oye continuas referencias al artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución española

me ha parecido que iban a pedir su aplicación el señor arraiz ha sido mucho más expreso porque ha dicho bueno no mandan ustedes tanques que entiendo lo que a usted le pone y le hubiera gustado que se hubiera mandado tanques

prácticas no precisamente democráticas y que mandan jueces claro en un estado de derecho van los jueces a resolver los problemas jurídicos claro

que los problemas jurídicoslo dirimen los jueces no los tanques que las discrepancias políticas se resuelven en los parlamentos y políticamente no bombas y pistolas claro es eso señor arraiz lo van entendiendo ustedes

pero es eso exactamente ni tanques ni bombas ni pistolas política y jueces cumplimiento de la ley de las resoluciones de los tribunales y también las del tribunal constitucional a través de las herramientas que se dota como en esta reforma para que se cumplan sorprendente también la apelación

pero que vamos entendiendo ya y el círculo se va cerrando y ustedes también en esto lo están consiguiendo

partido nacionalista vasco a sus posiciones porque no en vano les van a votar a favor de esta

con lo cual creo que es lo que usted ha anunciado señor egibar van a apoyar la proposición no de ley de

se va cerrando el círculo vamos ya teniendo más información

que en cierta manera sí hay una nueva realidad

escúcheme escúcheme porque es importante que ustedes entiendan una cosa

cualquier estado de derecho se dota de herramientas para responder ante aquellos que saltándose la ley se lo quieren cargar esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta porque aunque a ustedes no les importe la ley

aunque ustedes crean que su determinación política está por encima del ordenamiento jurídico no es verdad ni el partido nacionalista vasco ni eh bildu ni nadie

del estado de derecho y de las normas de su cumplimiento obligatorio de las que nos hemos dotado todos los ciudadanos es importante que lo entiendan pero hay una nueva realidad que el legislador no previó

pero en cualquier caso lo que no previó es cuando se redactó la ley orgánica del tribunal constitucional eso no se previó que iba a haber

que estaban dispuestos a no hacer ni caso a las resoluciones del tribunal constitucional eso sí que es una nueva realidad

inédita en europa no hay ni un solo representante institucional de ningún gobierno que esté dispuesto a saltarse y a cargarse las resoluciones del tribunal constitucional ninguno esto en alemania les parecería una barbaridad y hablan de política

y hablan de política y tienen foros políticos para debatir y dirimir las diferencias

que un representante político estuviera dispuesto porque él lo vale

que del tribunal constitucional eso no había pasado y el estado de derecho se dota de herramientas para defenderse ante esa aberración porque eso

democrático y de derecho y no dirime el tribunal constitucional ahora que algunos portavoces han aparecido que les preocupa que el tribunal constitucional tenga que dirimir no sé qué cosas no se preocupen

dirime cuestiones jurídicas es el intérprete máximo de la constitución es el garante y quien tiene que velar por su ejecución y su cumplimiento de la ley y lo que está haciendo es dotarle de herramientas para que no se impongan sus voluntades sino que se imponga

de entender y termino señora presidenta como despedida si cabe al señor arraiz yo no me refería a la salud

de estos cuarenta años ha ido cambiando de nombres ha ido cambiando de estrategias ha ido cambiando incluso o matizando el discurso político en función de lo que les interesaba no no yo digo que usted es nostálgico de una época porque en esa época hace cuarenta años

no acataban la constitución y no acataban el estatuto de autonomía

que esa posición política justificaba la utilización de la violencia la utilización del terrorismo para conseguir esos fines políticos

y el estatuto de autonomía porque eta mató mucho más en democracia

porque hubo quienes no quisieron aceptar las reglas de juego que los vascos en este caso los vascos de las que nos dotamos para convivir
a algunos les parece mejor otros peor amaitu sémper jauna pero los únicos que justificaron

se pudiera derribar a base de bombas y de tiros quienes justificaron política y socialmente la existencia del terrorismo fueron ustedes y afortunadamente lo que quería decirle antes

apelaba a su nostalgia es que no lo han conseguido

y los demás lo que nos toca es de dotarnos de herramientas para perfeccionar el sistema
para mejorarlo eskerrik asko sémper jauna gracias señora presidenta maneiro

presidenta efectivamente señor sémper cómo hemos llegado a la situación actual cómo hemos llegado a esta situación en la que hay representantes políticos

dispuestas a saltarse la ley de manera impune quién es el responsable último de esta situación pues evidentemente no son los complejos de upyd que no los tiene sino que efectivamente es la trayectoria política y los complejos del partido popular

por eso hay dirigentes políticos que a día de hoy están dispuestos a saltarse la sentencia del tribunal constitucional esta es la realidad y por eso hay determinadas sentencias

ante la pretensión de algunos de saltarse la ley o la sentencia del tribunal constitucional algo habrá que hacer efectivamente es el gobierno el máximo responsable de hacer cumplir la ley y la sentencia del tribunal constitucional sin embargo pretende delegar esa responsabilidad en el tribunal constitucional por lo tanto lo que en el fondo pretende el partido popular es lavarse

porque ya digo ya hay instrumentos ya había instrumentos jurídicos para hacer cumplir la ley y la sentencia del tribunal constitucional sin embargo el gobierno de españa prefiere hacer como que hace algo para seguir sin hacer nada esa es

de cobardía y de chapuza jurídica y esto lo han dicho juristas y catedráticos de prestigio que lo han explicado perfectamente y desde luego también upyd y creo que no somos en relación a estas cuestiones por lo tanto si ponemos en duda esta reforma si la criticamos es porque creemos que tenemos argumentos jurídicos de peso como para criticarla por lo tanto es una chapuza tanto en las formas como en el fondo en las formas ya lo hemos dicho sin debate sin informe del consejo de estado

dónde se ha visto cosa parecida así es como ha actuado en este caso

en relación a las formas y una chapuza en relación al fondo y creo que en relación al fondo he explicado perfectamente bien en mi primera intervención por donde

ir las modificaciones legales en el caso de que fueran necesarias que no lo son si se quisiera perfeccionar y como he explicado yo que efectivamente esto es una chapuza jurídica porque le confiere una carga política al tribunal constitucional que le perjudica al propio tribunal constitucional y perjudica al propio estado de derecho español disiento con algunas cosas que se han dicho el objetivo del pp no era poder actuar contra la generalitat no es poder actuar contra la generalitat ya tiene instrumentos para ello es justo lo contrario es hacer como que se era contundente pero a la vez lavarse las manos es decir

ya tiene instrumentos ya tenía instrumentos de sobra el pp no pretendía nada de eso

un acto de campaña electoral y dar la sensación a determinadas personas de que efectivamente se era contundente y esto efectivamente es una muy incorrecta manera de actuar

a la propia democracia y perjudica a las propias instituciones del estado

permanentemente que existe un problema político en cataluña hay muchos problemas políticos en españa pero los problemas políticos se resuelven hablando se resuelven impulsando reformas legales modificando las leyes debatiendo acordando así es como se resuelven los problemas políticos pero también evidentemente y esto de primero de democracia hay que cumplir la ley porque sin ley

y a los nacionalistas vascos también en algún momento se les ha olvidado y no hace demasiados años por lo tanto crítica contundente a la reforma que se plantea y defensa

democracia último apunte nos anuncia el señor pastor iniciativas para la descolonización política de determinados órganos enhorabuena

todo ello y yo mismo en este parlamento efectivamente la justicia debe descolonizarse de los partidos políticos la justicia debe profesionalizarse

y el consejo general del poder judicial cuántas veces lo he dicho yo aquí y cuántas veces se me ha atacado por plantear

que hay que despolitizar los órganos reguladores el banco de españa el tribunal de cuentas los tribunales

bien ahora se nos anuncia que se pretenden llevar a cabo esas medidas lo veremos

o si efectivamente se tiene esa disposición de impulsar medidas para regenerar la democracia eskerrik asko maneiro jauna egibar jauna zurea da hitza

que niega y que prohíbe una consulta no quiere conocer la verdad no quiere conocer la verdad y lo de cataluña arranca de esa manera

después de una modificación estatutaria etcétera etcétera el gobernante que niega o prohíbe las consultas no quiere conocer la verdad

y hay que darle una solución política ustedes lo saben porque las voluntades democráticas de los pueblos se podrán retrasar se podrán impedir provisionalmente pero al final buscarán un camino no sé si será el desbordamiento democrático o qué

esa expresión democrática y mayoritaria en este caso del pueblo catalán y están haciendo ustedes uso retorcido de una herramienta de modificar

el tribunal constitucional para juzgar casos concretos y personas concretas y eso eso aquí y en sebastopol es

al servicio de un pensamiento político que es el del partido popular eskerrik asko egibar

que por un momento y tras la presentación de esta proposición no de ley que solo pedía la revisión de una examen del ega en este caso

con estupor que se había desatado la tormenta política como les digo exclusivamente por pedir la revisión de un examen de acreditación

mucha preocupación por pensar que en un país democrático que tiene una política lingüística democrática pudiera haber esencias intocables

afortunadamente hoy venimos a este pleno con un respaldo mayoritario sino total de esta proposición no de ley que me apresuro

a todas sus señorías y es que la política lingüística de nuestro país señorías tiene una base sólida una base que nos ha permitido desarrollar una importante línea de avance del euskera

de las lógicas e inevitables diferencias puntuales que han existido y existirán las fuerzas políticas de este país hemos sabido consensuar un núcleo de acuerdo lingüístico sobre tres pilares fundamentales el propio estatuto de autonomía la ley de normalización del uso del euskera

educativo decisivo y fundamental la ley de la escuela pública vasca sin esa base común consensuada no se podría explicar el enorme avance que el conocimiento y el uso del euskera ha experimentado a lo largo de estos últimos cuarenta años ni por consiguiente la rápida

principalmente entre los jóvenes en una cuestión como la lingüística donde los avances y retrocesos se suelen dar por lo común a ritmos relativamente pausados ello ha hecho que nuestra experiencia haya sido internacionalmente reconocida y bien valorada

en cierta medida similar a la nuestra lógicamente los socialistas vascos nos sentimos muy satisfechos de haber contribuido activamente

señorías hemos estado en todos los consensos lingüísticos sin embargo la existencia de esta base lingüística consensuada no elimina de un plumazo los problemas que requieren nuestra atención permanente con la intención de ir solucionándolos en la medida de lo posible

de forma casi invariable a lo largo del tiempo sin que

y por lo tanto sin que hayamos podido establecer soluciones adecuadas euskaltzaindiak euskararen ezagutza akreditatzeko

y el uso del euskera en todos los ámbitos sociales se viene constatando una evolución negativa

dichas acreditaciones la media de aprobados en todas ellas ga habe ivap no llega a un tercio de las personas presentadas

habrá personas y quizás grupos políticos que no vean un problema en año tras año los resultados de aprobados en el examen del ega ronden el veintitantos por cierto

últimamente pero los socialistas vascos somos firmes partidarios del avance del euskera y la extensión de su uso social que es señorías el gran punto negro de la política lingüística que hemos aplicado

no tiene ningún empeño en rebajar la exigencia del ega si es para medir la capacidad de un traductor o de un profesor de euskera pero resulta que el ega

a cualquier puesto de trabajo en las administraciones vascas

sí creemos señorías que hay que cuestionarse si resulta la medida más adecuada para calibrar los conocimientos lingüísticos que se requieren para

es del veintitrés coma treinta y tres por ciento con un mínimo del veintiuno coma cuarenta y ocho y un máximo del veintiséis coma cuarenta y nueve es decir

logra aprobarlo por eso vemos un problema y creemos que estos resultados no son aceptables habida cuenta de que los certificados de aptitud lingüística son instrumentos fundamentales para acreditar

el grado de dominio de una lengua para su reconocimiento tanto en el sector privado como en el público pero es que en el caso de euskadi la relevancia de este certificado

dado que el desarrollo de la política de normalización del uso del euskera ha llevado a extender el sistema de perfilación lingüística como exigencia a la mayoría de los puestos de trabajo de las administraciones públicas

y profunda de las pruebas de ega se deben establecer cuanto antes además las medidas correctoras que se deriven de esta evaluación es el objeto de esta proposición no de ley que señorías les presento hoy para su aprobación les presentamos la propuesta que realizamos

en nuestro sistema de obtención de acreditación lingüística y producir una mejora es cierto que a corto y medio plazo la necesidad de pasar una prueba lingüística para acceder a una plaza con perfil lingüístico

y que la trascendencia personal y laboral del ega y otras acreditaciones lingüísticas van a ir progresivamente decreciendo conocen sus señorías

aprobó el decreto de exención de la necesidad de acreditación lingüística

ese fue un paso revolucionario en el proceso de normalización de la lengua ningún país lingüísticamente normalizado exige

la superación de una prueba lingüística para acceder a los diferentes puestos de trabajo supone el país con razón que la cualificación general

lo hace en todo caso con las personas extranjeras que no hayan sido escolarizadas en su sistema educativo legez besteko proposamenaren

birpentsamendu hori dago hain zuzen ere beraren funtsean es cierto que la situación del euskera no llega a tal grado de normalización

en el que parecía razonable plantear la superación de una prueba lingüística para acceder a puestos de trabajos perfilados la extensión de la enseñanza en euskara

la generalización y mejora de la calidad de los materiales curriculares que la situación no sea ni de lejos comparable con la de entonces y puedan abrirse otras vías paralelas que no exijan siempre y en todo caso

entre el cero y el cien siempre hay situaciones intermedias en base a eso aprobamos el decreto de exención que anteriormente les he mencionado y que básicamente exime de la necesidad de acreditar

al alumnado que curse satisfactoriamente en euskera más de la mitad del currículo de la enseñanza básica y obligatoria

similar eximimos del bmenos dos a los que obtengan el título del bachiller

equivalente al ega en el caso de las titulaciones universitarias desde luego es una decisión tomada con toda la cautela porque la gran mayoría del alumnado que obtenga el grado secundario en las condiciones exigidas tendrá un nivel superior

pero sin riesgo alguno se puede asegurar que sin necesidad de una prueba lingüística adicional todos ellos superan sobradamente ese nivel como les decía señorías y voy terminando

va a ir limitando progresivamente el número de personas que se tengan que presentar al examen de ega y de otras certificaciones lingüísticas

sigue todavía son miles los aspirantes que se presentan a las pruebas de ega con resultados decepcionantes en la mayoría de los casos el problema sigue y hay que prestarle solución y atención

esa transacción y de verdad porque se ha ido ha sacado otros debates se ha ido un poco los cerros de úbeda nosotros

estrictamente la cuestión vamos a apoyar esa enmienda que han firmado los principales grupos de la cámara porque entendemos que solo con

proposición no de ley por la señora celaá esas cifras del setenta y cinco por ciento del ochenta por ciento de fracaso en las pruebas de ega también se hace referencia a las pruebas de acreditación en habe ivap etcétera en determinados niveles se nos ha recordado incluso

de fracaso o menos del diez por ciento superan esas pruebas solo con esos datos yo creo que tenemos todos que coincidir en la necesidad de reformar el sistema para la acreditación oficial del conocimiento del euskera es necesario

la necesidad de revisar esas pruebas de analizar exactamente qué es lo que está pasando porque no resulta comprensible que efectivamente ese nivel de fracaso esté afectando incluso a euskaldunes a personas que han desarrollado toda su etapa educativa

y por tanto creemos efectivamente que resulta urgente conocer exactamente cuáles son las causas si es un problema

de las pruebas de la preparación recibida necesitamos saber y conocer exactamente

creemos que es positivo que se analice esa orientación los contenidos de las pruebas y que se presente a este parlamento de una vez por todas un análisis

que se aporten las mejoras que se consideren oportunas en relación con las pruebas y también con lo que tiene que ser la adecuación y la exigencia lingüística

a las funciones a desarrollar por parte de esos funcionarios yo creo que eso también es un debate que se debe abrir en paralelo a lo que es el análisis de esas pruebas

esta enmienda de transacción que no hemos firmado pero consideramos que persigue los objetivos que nosotros compartimos nada más y muchas gracias eskerrik asko

dos cosas por un lado que este parlamento inste al gobierno a constituir un grupo de estudio formado por expertos de distintos ámbitos para que

de las pruebas de acreditación oficial del conocimiento del euskera especialmente del ega y por otro lado propone que dicho grupo de estudio proponga los cambios que considere

de las experiencias con otros idiomas para adaptar las pruebas a las necesidades presentes de la sociedad vasca y favorecer

del uso del euskera en relación a la justificación del grupo socialista señala que se viene constatando una evolución crecientemente negativa en los resultados que se obtienen en las pruebas para conseguir las acreditaciones lingüísticas cosa que efectivamente como se ha dicho no es del todo cierta ya que en años anteriores los resultados fueron todavía peores señala también en su justificación que la media de aprobados en la gran mayoría de esas pruebas no llega a un tercio

se queda en el diez por ciento señala que en el caso del ega

logra aprobarlo y señala que no resulta comprensible este nivel de fracaso y que esta realidad causa frustración sufrimiento compara los resultados de estas pruebas con los resultados de otras pruebas en otros idiomas y yo creo que efectivamente como también se ha dicho no es comparable

lingüística y sociolingüística de cada lugar y evidentemente está claro que la realidad sociolingüística de euskadi es peculiar es singular y es muy diferente a la sociedad lingüística y a la realidad lingüística de otros lugares propone

ante esta realidad y concluye señalando que resulta urgente aclarar si este nivel de fracaso se debe a causas achacables a los aspirantes o a la preparación que han recibido

de las pruebas mismas añado que puede deberse a otros factores como decía antes como la realidad lingüística existente en euskadi

diversas cuestiones que yo quiero poner encima de la mesa cómo favorecemos la extensión del uso del euskera

las excesivas exigencias lingüísticas en las distintas administraciones y organismos dependientes de ellas los bajos niveles lingüísticos de los alumnos que han cursado sus estudios

de la presión lingüística y todas estas son cuestiones que en mi opinión son muy interesantes la idea que surge de la propuesta socialista es la siguiente

analicemos estos resultados y las razones que están detrás de estos resultados a mí esto me parece en principio bien pero corremos un

corremos el riesgo de que lo que se pretenda plantear

dado que los resultados de las pruebas de acreditación son muy bajos o son muy malos bajemos el nivel de exigencia de esos exámenes para que haya más aprobados y esta reflexión nos parece muy simplista yo prefiero que respondamos a otras preguntas o al menos que podamos hacérnoslas no pretendo tanto por lo tanto en este caso responder a todas estas preguntas sino al menos plantearlas para la reflexión de todos ustedes y de un servidor

es razonable que en tantos puestos de trabajo de la administración pública se exijan conocimientos lingüísticos y tantos conocimientos lingüísticos o conocimientos lingüísticos

alcance unos conocimientos lingüísticos en muchas ocasiones

cómo favorecemos la extensión del uso social del euskera de qué modo es razonable pretender favorecer la extensión del uso del euskera vía empobrecimiento de la lengua vasca cuál es el nivel verdadero real que se habla de euskera

no será que los resultados de los exámenes lingüísticos lo que ponen de manifiesto es la cruda realidad de los hechos ciertos esto es que el nivel que se habla en muchos casos es claramente mejorable es decir que igual resulta que la gente que suspende el ega suspende el ega porque no tiene el nivel suficiente para aprobarlo qué hacemos para que el uso del euskera se extienda

mejore y que cada vez haya más gente que lo hable y que además que haya cada vez más gente que lo hable mejor y también cómo hacemos

y a los abusos que se siguen cometiendo en aras de la sacrosanta

lingüística mis abuelos maternos apenas sabían castellano únicamente sabían euskera prácticamente y se desenvolvían prácticamente siempre en esa lengua que hablaban mucho mejor en euskera que en castellano

que no era conveniente enseñar euskera a sus hijos por aquello de que en aquella época aparte de que había ciertas limitaciones

también porque se hacían el planteamiento de que el euskera en ciertos sectores de la población estaba mal visto pero esto es una realidad por otro lado yo soy un euskaldunberri he estudiada en euskaltegi he estudiado en barnetegi muchos años

no alcanza el nivel suficiente como para aprobar el ega por otro lado alrededor mío he convivido con personas que han sufrido

evidentemente han presentado sus denuncias correspondientes por otro lado soy una persona que a su hija pequeña le habla siempre en euskera

y efectivamente suspendí y además suspendí no porque el examen estaría mal planteado o mal hecho sino porque efectivamente no tenía el nivel suficiente para ello

personal y cuáles son las vivencias que yo he tenido en relación al euskera y teniendo en cuenta todo esto yo creo al menos dos cosas

sobre todo dos cosas creo que los malos resultados de las distintas acreditaciones lingüísticas evidencian una realidad que las personas que suspenden

para aprobar esas pruebas y creo también sinceramente que el nivel de euskera que se habla en la calle es claramente mejorable evidentemente está muy bien que cada vez haya más gente que lo hable pero creo también interesante que es

de mayor calidad y a la vez que creo esto también creo que se exigen conocimientos

para acceder a los distintos puestos de trabajo de la administración ciertamente son dos cosas distintas una cosa es el nivel de euskera que se valora en las distintas pruebas

en todos los puestos de trabajo de la administración pública o que sea exigible un determinado nivel de euskera y ciertamente teniendo en cuenta todo esto la enmienda que nosotros hemos presentado qué es lo que nosotros planteamos en nuestra enmienda instar al gobierno vasco

realmente necesarios únicamente en aquellos puestos de trabajo donde esos conocimientos lingüísticos sean estrictamente necesarios para realizar correctamente la labor que exige el puesto de modo que no se puedan seguir produciendo discriminaciones y abusos por razones lingüísticas

bajo la excusa inaceptable de la llamada normalización lingüística este es un asunto que efectivamente el resto de grupos no ha querido tocar pero que creo que debería en un asunto como este en todo caso hay una transaccional y esa transaccional ciertamente me parece bastante razonable lo que se propone me parece bastante razonable que se analicen los exámenes que se analicen cómo se hacen los exámenes que se analicen las pruebas de acreditación que se analice

aprende euskera el nivel de euskera que se habla y que efectivamente a partir de esas conclusiones esas conclusiones puedan ser presentadas en el parlamento

se tomen la decisiones adecuadas esto por lo tanto me parece razonable y por eso

hay un asunto que se mantiene o que ustedes han decidido mantener al margen del debate y

que todavía existen en euskadi por cierto lo importante es

pueda hablarlo y que lo hable además de la mejor manera posible es decir que pueda expresarse de la mejor manera importante de la manera más correcta posible y no tanto la acreditación

que terminen cuanto antes los abusos y las discriminaciones lingüísticas gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria mendizabal andrea zurea da hitza

decirle que efectivamente si tuviéramos un país en el que

y se hablara por igual y se conociera por igual y se leyera por igual no estaríamos hablando de esto no estaríamos hablando de esto pero solo recordarle un par de datos en el año ochenta y cinco cuando se hace el estudio de siadeco

era bilingüe era euskaldun un cinco por ciento hoy es más del noventa y siete por ciento

en la enseñanza no universitaria y del alumnado tan solo eran euskaldunes aquellos que procedían de

veintidós por ciento y soy optimista sin embargo hoy podemos decir esta es la encuesta sociolingüística

un cuarenta y seis coma ocho por ciento de personas entre dieciséis y veinticuatro

son bilingües todo esto lo ha hecho el sistema sobre todo la escuela y claro la escuela está trabajando denodadamente con el euskara como lengua preferente con el euskara como lengua preferente

son apenas el tres coma y pico por ciento pero es que además aunque

va evolucionando resulta que

también suspende el ega por tanto aunque no hemos conocido y no conocemos or eso no sé por qué la señora mendizabal dice

aunque no conocemos los perfiles de las personas porque no lo hemos estudiado

y lo suspenden y lo suspenden luego aquí habrá que ver efectivamente señor maneiro aquí hay varias cosas y hay varias cosas también que usted ha leído un poco por encima porque no solo estamos hablando del nivel del examen y no estamos hablando de reducir el nivel

estamos hablando de orientar el nivel del examen es decir si queremos un resultado práctico de impulsar el uso que parece que es

nuestra debilidad pues habrá que orientarlo de esa forma pero si queremos que el ega solamente sea para traductores y para profesores de euskera

pues pudiera ser pero claro el ega no se adecua a las funciones que ha de desempeñar quizá o que se le exige desempeñar en algunos

pero si usted se fija en el segundo párrafo también dice

por tanto esto no se ha escapado del texto está en el texto

su importancia por lo tanto no estamos hablando de sencillamente una reducción estamos hablando de otras muchas cosas agradezco al señor oyarzabal su apoyo a esta propuesta y efectivamente no es una cuestión del ega solo cómo va a ser pero el ega

ha sido precisamente el articulador de toda su puesta en marcha el catalizador de la puesta en marcha del gobierno probablemente lo tendría en la mente no digo que no pero ciertamente si asistimos a todo lo que pudimos leer a partir del momento

pero qué tiene que ver decían puede haber personas que hablen perfectamente y desarrolle su vida en euskera y sin embargo no aprueben en ega y otras muchas cosas pero el problema

el ega es el examen con el que la gente se juega

o no tenerlo o conservarlo o no conservarlo esta es la diferencia porque fíjese usted usted me puede decir que el ce uno obtiene parecidos resultados pero es que no me preocupa

el ce uno ni en euskera ni en inglés ni en parecidos porque el ce uno no es el examen

y esta es la cuestión esta es la cuestión precisamente por eso lo traemos aquí y nos alegramos además de que a pesar de todo sus trabajos señora mendizabal n poquito de humildad hombre que no pasa nada dice ustedes están trabajando desde siempre y tal oiga pues para la respuesta que nos dieron en un primer momento no parecía pero era igual si lo importante es avanzar en conjunto grupos aislados no vale para conseguir el resultado final

uno más un catalizador más no importa lo importante es el resultado

para bien de todos y para conseguir efectivamente cada día más un país normalizado lingüísticamente es decir bilingüe más inglés eso es lo

defecto en la redacción lo que pretendíamos era decir lo que yo he dicho en mi intervención adecuar efectivamente esas pruebas al nivel de exigencia y a la exigencia que

van a tener las funciones que van a tener que desempeñar en su trabajo
los funcionarios nada más muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

si les propusiéramos realizar una prueba de castellano a algún alumno de algún centro de euskadi

su abuelo opinaba que no se enseñara el euskera entre apuntes y tal algo así ha dicho

decidió libremente eso quiero decir el contexto en el que vivió más o menos todos sabemos

entonces la sociedad vasca va por delante la mayoría de las personas

para acceder a determinados puestos de la administración y eso lo dicen las encuestas

y señor maneiro el nivel de euskera de la calle seguramente es mejorable y

y a lo mejor incluso más señora celaá

porque para dar lecciones de algo hay que serlo primero y ahí lo dejo de todas formas ha conseguido usted ser la protagonista una vez más sobre este tema le han dedicado páginas enteras en los medios de comunicación escritos

en dichas páginas le han reprochado además que siendo usted consejera de educación

o que los posteriores y que siendo usted consejera de educación y teniendo en su mano todos los resortes para ello no tomó ninguna decisión al respecto pero bueno es humano darse cuenta muchas veces a toro pasado y cada grupo tenemos aquí el derecho y la legitimidad para presentar cualquier propuesta faltaría más

que se requiera el ega para acceder a cualquier puesto de la administración la relación de puestos de trabajo de una administración especifica claramente qué perfiles lingüísticos qué porcentaje en cada administración según el nivel de vasco hablantes que

no lo mitifique nuestro objetivo

nuestra labor deberá ser por ello pensar en crear las condiciones idóneas para que dicho uso y aprendizaje se extienda realizar una labor de concienciación y de accesión a favor de la lengua una tarea de prestigiar la lengua

por ello quiero lanzar una pregunta a todos los grupos creen ustedes que con el debate que hemos tenido esta mañana y con debates parecidos en anteriores ocasiones sobre este tema
hemos contribuido en algo a favor del euskera que cada persona en conciencia se responda a sí misma eskerrik asko eskerrik asko